muy brevemente comentaros qué hemos hecho con las abundantes proposiciones que han hecho los distintos grupos

cuál ha sido el espíritu que nos ha caracterizado la verdad es que lo primero hay que agradecer el esfuerzo que todos y cada uno de los grupos han hecho para intentar

en casi todas las proposiciones nuestra actitud es con los ciento quince de bildu

con el pp cuatro vamos a decir que no

con el gobierno con socialistas vascos y nacionalistas vascos hemos hecho diez abstenciones y dos transacciones y no hemos dicho que no a ninguna

caracteriza a elkarrekin podemos es llegar a acuerdo con los cinco grupos puesto que insisto en el tema lo he dicho ya tres veces hoy esto es un tema de consenso es lo que se espera de nosotros no estamos para tonterías como están los tiempos por lo tanto

en llegar a máximos acuerdos con todos los grupos

algunas cuestiones de no que parece fuerte con algunas fuerzas políticas en bildu hemos dicho que sí vamos a votar que sí a las ciento quince menos a cuatro de ellas que décimos que no porque la veintiocho la veintinueve treinta y treinta y uno

que en nuestra opinión están en acuerdos más amplios más transversales más profundos y más concretos en concreto en acuerdos de este parlamento vasco

y del dos de noviembre del dos mil diecisiete sobre exactamente el mismo tema por lo tanto parecería que es una redundancia

meterlo como propuesta de resolución en el punto dieciocho hemos dicho que no porque plantea un decreto para el acercamiento y nosotros décimos zertarako para qué un decreto

para qué hace falta un decreto preguntamos bien no lo entendíamos bien y hemos dicho que no

con el pp tenemos un problema vemos que han hecho un esfuerzo y que realmente han hecho veinte proposiciones de transacción de resolución de carácter

yo agradezco el esfuerzo de la parlamentaria nerea llanos

discute la comisión mixta gestiona el proceso de transferencia pero realmente las transferencias están en el estatuto está en el diez punto uno doce punto uno diez punto cuatro y diez punto uno del estatuto de autonomía

gestiona el proceso de transferencia y no es necesario más vistos buenos por eso a la uno hemos dicho que no

que la formulación que es de carácter general como bien sabe la parlamentaria llanos pues a veces se olvidan de algunas orientaciones una orientación básica para nosotras y para nosotros como es

la reinserción y no solamente en procesos de rehabilitación que parecerían

nos hemos abstenido no pasa nada pero hay un tema que sí quiero comentarle a la parlamentaria llanos es el punto catorce en el punto catorce plantea la atención específica a las mujeres bien no hay problema

no es un asunto específico del colectivo de mujeres es un asunto transversal del proceso de gestión de la prisión por qué digo un proceso transversal porque los espacios están muy masculinizados porque las actitudes machistas del conjunto de la gente que convive en prisión de los hombres que conviven en prisión es obvio porque

no es solamente formularlo de forma general merece la pena más concreción solamente esas cuestiones

insuficiente y en el tema por fin y acabo

no a ninguna porque son asuntos que estamos de acuerdo pero quería plantear algunos temas

pero quería hacer dos hincapiés en algunos temas que nos parecen preocupantes uno

del tercer sector es el tema del punto treinta y seis el tercer sector no es responsable

es responsable la administración pública y ese tema no queda claro

la administración pública el parlamento vasco el gobierno vasco la consejería de la consejera maría jesús san josé supervisa

evalúa y subvenciona no es el tercer sector solamente y específicamente responsable de sus actividades creemos que no queda claro ese asunto en el punto treinta y seis estamos de acuerdo lógicamente no décimos que no

que queríamos comentar el tema de las unidades especiales anexas para el tratamiento psiquiátrico compartimos con el

y con la colega castelo el planteamiento del punto cuarenta y cuatro ya lo comentamos ayer sin embargo no se trata tanto de tirar de las unidades psiquiátricas

nosotros necesitamos organizar fórmulas nuevas de unidades especiales de tratamiento para los trastornos mentales graves y dice hombre que lo haga

pública o concertada que lo haga aita menni no tenemos otra cosa que lo haga

no no estamos de acuerdo con hospitales psiquiátricos que tengan unidades especiales ya se ha experimentado y no ha funcionado no estamos de acuerdo con

como el de alicante como el de sevilla no funcionan estamos por unidades en el marco comunitario

en el marco comunitario o en marcos específicos para el tratamiento de las enfermedades mentales graves y el punto cuarenta y cuatro que han planteado

hacen una especie de vamos a tirar de lo existente para dar salida a este tema del tratamiento de enfermos mentales

que es una humilde abstención estamos también en otro tema como es el tema de la cuestión del treinta y cuatro

los delitos del narcotráfico los delitos del narcomenudeo que se llama eso tenemos que prever o tenemos que prever

camellos los grandes marchantes los que controlan el mercado del delito

diréis hombre a estas horas de la tarde jota no te pongas tan fino

nosotros y yo creo que todos y todas aquí estamos por prever los delitos de narcotráfico de gran escala los responsables

los responsables del tema del delito del narcotráfico que por supuesto estamos de acuerdo por eso no décimos no a que hay que hacer políticas de prevención del narcotráfico que lleva a la gente que luego

es un tema de responsables del mercado del narcotráfico bien y por último solamente un asunto que me parece

se plantea en el punto diecisiete que nos vamos a abstener también la congestión de los reclusos

en los procesos en las instalaciones y en los procesos de trabajo internos en la prisión bien no pasa nada estamos de acuerdo lo firmamos mañana sin embargo a estas alturas de la película y con más de ciento setenta proposiciones de resolución

que la cogestión es difícil de trabajar con gente que no tiene contrato de trabajo

cuando estamos hablando de empleo perdona por la redundancia de empleo de los reclusos y reclusas estamos hablando de contrato de trabajo remunerado entonces si estamos hablando de contrato de trabajo remunerado y no voluntariado que también

hablar de cogestión es un término un poco complicado de manejar bajo el punto de vista laboral bajo el punto de vista humano bajo el punto de vista de las fórmulas de tomas de decisiones la cogestión con gente

difícil bien este es el asunto nos parecen cuestiones algunas de tipo formal de más calado que son las que estoy intentando explicar me alegro en sobre manera que de las aproximadamente

elkarrekin podemos ha dicho sí a más del ochenta por ciento y en principio por lo que sabemos de las opiniones del conjunto de los grupos

lograr que los cortes que hace la prensa de este pleno los cortes mediáticos de este pleno sean cortes que tienen que ver con las aspiraciones de la gente que es la gestión de la seguridad es la gestión de otro modelo de cárceles

y es que se cumplan las leyes eskerrik asko eskerrik asko uria jauna

alde bozkatzeko daudela sartzen garenean zehaztasunetan y por qué pues porque mandamos trabajos concretos muy concretos a muchos departamentos del gobierno vasco a seguridad a salud a educación a políticas sociales a economía y hacienda al ivap

y cómo no al departamento de justicia y trabajo en las dos partes que tiene ese departamento y por qué hacemos eso porque

con la nueva competencia evidentemente van a cambiar las cosas tienen que cambiar y van a cambiar y habrá situaciones nuevas momentos nuevos a los que habrá que dar respuesta y habrá de adaptarse a esos momentos situaciones nuevas y por eso proponemos hasta diecisiete formas de dar respuesta a esas actuaciones proponemos un mecanismo vasco de prevención a la tortura y a los malos tratos

un observatorio público independiente del sistema penal un plan para la creación de módulos familiares para la convivencia de parejas con hijos menores de tres años

de los y las profesionales del servicio ejecución de penas un plan de readscripción o reasignación de los y las funcionarios de prisiones y cómo integrarlos en la administración vasca cuerpos propios técnicos de especialistas penitenciarios

programa de intervención para la progresión del primer grado al segundo

es decir cómo se ayuda a las personas que salen

en sus primeros momentos sistema de evaluación de riesgos para el régimen abierto

diagnóstico sobre la adecuación de los programas educativos a la situación penal de cumplimiento protocolo de estudios universitarios con la upv y el departamento de trabajo y justicia

plan de educación para la comunicación y pedagogía de la prisión eta hemen utziko dut

es que son muy concretas que bajamos mucho a la concreción y que como bajamos mucho a la concreción

que en su momento ya veremos lo que hace el gobierno vasco es decir que lo que se nos está diciendo es que somos muy ambiciosos y que queremos hacer muchas cosas

con los presos de motivación política presos políticos presos que la señora llanos llama no sé qué es decir con unas concretas personas cuatro propuestas

porque son propuestas que tienen que ver con el fin de la excepcionalidad en la aplicación de las normas con el fin de la dispersión estas son las propuestas y hay una que efectivamente sí que podría haber resultado igual un poco más complicada de aceptar y lo entiendo perfectamente hubiera sido posible hablar de ella y retirarla o hacer una transacción o incluso quitarla pero nadie nos lo ha propuesto porque nos hemos quedado en otras cosas la que tiene que ver con los familiares fallecidos con motivo de la dispersión bien podríamos haber hablado de eso pero nadie ha querido hacer eso pero es que además muchas de esas propuestas están recogidas aquí aquí en el plan de convivencia y derechos humanos dos mil diecisiete dos mil veinte plan del gobierno vasco

se nos dice que no se pueden aprobar yo creo que cuando se han leído este trozo no se han puesto las gafas de leer se han puesto las gafas de visión corta y se han puesto las gafas de discurso fácil eta

artikulu batzuk daude eta erregelamendu honetan esaten da capítulo quinto sección segunda de los debates monográficos artículo ciento noventa y seis cuando lo solicite el gobierno

desarrollo de los debates artículo ciento noventa y ocho si se celebrase el debate a petición parlamentaria se iniciará con la intervención de los representantes de los grupos

del artículo anterior y los apartados tres a siete señalan

concluido el debate se abrirá un plazo de hasta dos horas para la presentación de propuestas de resolución por parte de los grupos parlamentarios la mesa competente admitirá aquellas que sean congruentes con las materias tratadas en el debate y dará traslado de las admitidas a los grupos

emango edo transakziorik ez dugu egingo itzulpen sistema ez du funtzionatzen mesedez si no hay defecto de forma porque la mesa las ha admitido lo que está claro es

el problema es que igual lo que pasa es que no se quiere que no se quiere aprobar esas propuestas con esos contenidos y entonces ya el debate

el debate es de fondo y se utiliza la forma para

se puede si hay voluntad se puede hacer eta proposamen horietan dago gauza bat

señor uria la verdad es que esta mañana no he podido contestarle porque es verdad que usted aquí hablando

de lo que a este parlamento o en este parlamento incluso aunque se produjese la transferencia se podría debatir usted esta mañana y ahora ha intentado continuar nos ha hecho una teoría como si estuviéramos en una clase a mí me recordaba como si volviese a la universidad una teoría

a los distintos delitos y bueno pues usted

y a la tarde ha hablado también del tema del tratamiento del narcotráfico del tema penal del tratamiento a los

a los grandes traficantes o a los pequeños traficantes

en esa teoría de la respuesta punitiva del estado

no estaríamos de acuerdo y en algunas cuestiones pues no sé a lo mejor estábamos de más de acuerdo porque yo creo

en el que desgraciadamente todos los días tenemos un episodio como son las mujeres víctimas de violencia de género pues ya me contará usted qué respuesta se le da a esos delincuentes y asesinos si no es la cárcel

como he dicho a la mañana y no podía ser de otra manera porque así lo recoge el artículo veinticinco de la constitución deben de ir dirigidas a la rehabilitación y a la reinserción es decir a esa prevención especial a intentar evitar que el penado vuelva a delinquir y a darle los instrumentos y las habilidades necesarias en prisión precisamente para esa rehabilitación para esa reinserción y que cuando salga esté en mejores condiciones que cuando fue condenado pero también es cierto

de las misiones de la pena es la prevención general y es que

a esta cámara y puso un ejemplo muy concreto que es por ejemplo en los temas de seguridad del tráfico de penas que se imponen y que continuamente se están incumpliendo

bien se están incumpliendo continuamente cuando se accede qué ejemplo se le da a la sociedad y lo dijo así qué ejemplo qué le décimos a la sociedad si directamente esa persona pasa ya al régimen abierto pasa ya al tercer grado y lo dijo así y ahí en esa visión está absolutamente

general y nosotros en nuestras propuestas de resolución hemos intentado ser muy concretos es verdad que a veces las respuestas de resolución pueden ir más adornadas pueden ir más con más

yo antes y nuestro grupo antes de hacer las propuestas de resolución nos hemos mirado todas las comparecencias que aquí hubo que nos parecieron interesantísimas porque todas intentaron aportar

de esas deficiencias o de esas cuestiones que aquí se planteaban en esas comparecencias hemos ido

de nuestro grupo como he dicho esta mañana y es la primera de las propuestas que presentamos es el gobierno de españa y el gobierno vasco en el seno de la comisión mixta de transferencias la que debe de acordar la transferencia de la competencia de instituciones relativa las instituciones penitenciarias y cuando se den las condiciones sociales oportunas

pues no estamos porque no estamos de acuerdo con ello

ya se lo hemos ya lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones pero son ellos los que tienen que acordarla como decía

de las penas pues debe contribuir efectivamente a la rehabilitación y la reinserción y a potenciar el tratamiento penitenciario con el fin como decía antes de dotarle de herramientas que les ayude a afrontar su salida de prisión y que cuando vuelvan

como nos han puesto de manifiesto muchos de los comparecientes muchos internos proceden de ámbitos de exclusión social y en muchos casos han delinquido precisamente por proceder de esos ámbitos de exclusión social porque no han contado ni con los recursos ni con las habilidades suficientes

que les permitan no volver a reincidir y rehabilitarse en el sentido de que

delitos como décimos debe de basarse en la rehabilitación y reinserción pero también

de la población reclusa de toda la población reclusa del daño causado de responsabilidad con la víctima y con el conjunto de la sociedad y esa responsabilidad con todas las víctimas de todos los delitos

por la condena y que las instituciones penitenciarias deben velar por ello

he dicho esta mañana en mi primera intervención la propia ley orgánica general penitenciaria

un mal necesario pero no podemos pecar de buenismos para algunos delincuentes la cárcel debe de existir es un mal que en la medida de lo posible debe evitarse sí pero para algunos delincuentes

pero también es cierto que como mal necesario como digo la propia ley orgánica general penitenciaria lo prevé el sistema penitenciario debe de ayudar a crear las condiciones idóneas para reducir

medios personales y materiales en el tema de los medios personales lo he dicho esta mañana

que no ha quedado muy claro la evolución que ha tenido el sistema penitenciario español en parte ha sido gracias a los funcionarios a todo ese personal que ha trabajado en las instituciones penitenciarios y que pone todo su empeño y todo su trabajo y cuya labor

amenazados y en muchos casos han sido blanco de la banda terrorista eta

por ser funcionario de prisiones y como digo gran parte de la evolución que ha tenido ese sistema penitenciario ha sido

un sistema individualizado y en función de esa individualización debe establecerse cuál es el tratamiento dirigido para conseguir esa rehabilitación y reinserción y dotar a cada recluso de los recursos sociales sanitarios formativos y laborales convenientes también hemos propuesto que

de respeto que son valorados muy valorados internamente y externamente

el trabajo que ha hecho las entidades del tercer sector ha sido mucho y ha sido muy importante

en el que se integre los equipos directivos de los centros penitenciarios vascos

que trabajan con la población reclusa también es necesario y por ello también hemos presentado una

ayuntamientos y las propias instituciones del tercer sector para evitar disfunciones lo hemos dicho

cuando fuimos a zaballa vimos dos casos palmarios

ese recluso mayor de noventa años que continuaba porque no había un recurso social o el enfermo de cáncer que no tenía tampoco una dotación a la que poder ir por ello creemos que se debe llevar a cabo que también fue solicitado por alguno de los intervinientes

de los perfiles de los internos que pueden acceder a los mismos con el fin de que puedan ser

cuando por ejemplo nos habló de que existen pisos que están destinados a enfermos de sida que cuentan con plazas libres en este momento porque el vih ha disminuido mucho en las cárceles pero a las que no se puede erigir otro tipo de enfermo porque el recurso

para personas afectadas por el vih también es preciso coordinar el tratamiento dentro de la cárcel con los servicios prestados fuera de ella y teniendo en cuenta

más vulnerables indudablemente un factor importante para la integración y la rehabilitación para dotar de capacidades a la salida de prisión es la educación por ello el sistema penitenciario debe trabajar en la educación y en la formación de

a través de los programas de educación de adultos de la formación universitaria a través de la uned y del acceso a la formación profesional

con el que cuenta la población reclusa y un instrumento imprescindible para su resocialización y la integración a la salida de prisión

desde el sistema penitenciario se deben fomentar esos hábitos laborales que la población penada

continuidad cuando este fuera de prisión el colectivo de mujeres

se ha dicho aquí y como hemos escuchado en las ponencias las cárceles son lugares masculinizados y el sistema tiene una dimensión masculina que es necesario cambiar también pues tendríamos que estudiar yo no creo que se creen inmediatamente pero sí estudiar

la convivencia con menores de tres años fuera de la cárcel porque no es el mejor lugar para los menores

han sido las personas comparecientes que han puesto sobre la mesa el problema del elevado volumen de personas reclusas en euskadi con enfermedad mental personas a las que debe darse un tratamiento

estudiar la ampliación de las unidades psiquiátricas en dicho estudio debe tenerse en cuenta

ha habido opiniones en los dos sentidos de si el tratamiento debe hacerse en unidades específicas dentro de la cárcel o unidades propias del sistema de salud también desde el sistema

población reclusa drogodependiente con la mejora de los recursos y módulos destinados a los mismos y también tenerse en cuenta aquellos internos con penas elevadas y por lo tanto desarrollar medidas específicas a esta población reclusa el servicio de penas como hemos oído en las comparecencias

y materiales de dicho servicio para que realmente cumpla la finalidad pretendida

un estudio de las infraestructuras existentes pero llevarlo ya no cuando venga la competencia sino antes ver

si hay que cerrar alguna si tenemos que abrir más

lo decía también esta mañana hay quienes consideran que solamente es necesario un centro de cumplimiento en zaballa y en los otros dos territorios

sería una irresponsabilidad llevar a todos a zaballa concentrar allí toda la población

no existiese dos establecimientos para

ordinario debiera por tanto como décimos analizarse las infraestructuras y ver

si se tiran si se construyen otras nuevas y en caso de que se construyan otras nuevas de qué tipo y de qué dimensión

con relación a las propuestas de otros grupos

con relación a bildu yo le voy a ser sincera yo voy a votar que no nosotros vamos a votar que no a todas

la visión que tienen ustedes y no desde luego desde el punto de vista formal y estoy de acuerdo con usted que creo que a las nuestras nos va a pasar parecido yo creo que si no estuvieran bien redactadas solamente porque le falta esa

está claro que son las propuestas que cada grupo tienen con relación al asunto

todas sus medidas van dirigidas no a la transferencia de prisiones van mucho más allá

un modelo propio estableciendo con el que en algunas cuestiones se cumple como no podía ser de otra manera lo que el sistema penitenciario español establece pero con una finalidad de tener su propio sistema que va más allá en muchos casos la transferencia no les sirve porque no les es suficiente y yo le decía y luego en el foco usted dice que no aquí es muy hábil y en un debate parlamentario pues es muchísimo más o queda muchísimo mejor o llámele usted como quiera señora

que su objeto de preocupación es toda la población reclusa todos los presos la situación penitenciaria

en lo primero de lo que hablaron es lo primero los presos

que yo llamo usted ha dicho que la señora llanos llama no sé qué no yo no le llamo no sé qué yo le llamo lo que son terroristas

que no están en la cárcel por temas políticos que no son presos de motivación política que no están en la cárcel por hacer política

el partido socialista y el partido popular por hacer política

la señora castelo esta mañana hemos tenido nuestros derechos mucho de nuestros derechos muy limitados pero los presos de eta están en la cárcel por pertenencia

por ser terroristas por ser asesinos secuestradores extorsionadores

delitos y yo sí le he puesto esta mañana que una de sus medidas

que una de las medidas precisamente era considerar a los familiares víctimas de la política de estado

la política penitenciaria a favor de su parroquia a favor de quien

todavía a día de hoy no han condenado y si mañana ponemos sobre la mesa aquí una iniciativa para que condenen a la banda terrorista eta y el pasado de la banda terrorista eta ustedes

me gustaría que fuera otra pero desde luego sería no condenarla no condenarla porque siguen en las mismas que han seguido siempre con relación

ya se vienen realizando y con relación a las del partido nacionalista vasco y el partido socialista

de sus propuestas de resolución

sí no si muchos servicios ya están transferidos de lo que habla el artículo diez punto catorce es ejercer la competencia

pareciera que con esta redacción ustedes renuncian a las instituciones penitenciarias y que solamente les valen con los servicios que muchos de ellos ya los tienen

con relación al resto tenemos dos grupos en algunas de las cuestiones

son coincidentes con las nuestras y en otras pues votaremos que no porque

a la justicia restaurativa tal y como está diseñada creemos que es algo

más difícil de integrar y porque

no estamos de acuerdo nada más muchas gracias eskerrik asko

buenas tardes el grupo socialista lo primero que quiere hacer en esta intervención destacar que al margen de las diferencias que hemos venido manifestando en el debate

resaltarlo un modelo con vocación social y en el que utilicemos nuestras competencias las presentes y las que esperamos que lleguen hacia el fin de la reinserción que establece la constitución les decía esta mañana que lo importante en este debate era que consiguiéramos algo útil

lo son porque entran en lo fundamental pero lo son también porque reflejan un consenso amplio y las cosas que quieren durar en el tiempo merecen ese amplio suelo compartido sobre él luego lógicamente se podrán introducir mejoras

claras queremos que se materialice la transferencia de prisiones en los términos previstos en el estatuto por eso no podemos compartir la enmienda del partido popular

hay un estatuto nosotros defendemos el autogobierno defendemos la necesidad de complementar ese estatuto y por tanto las condiciones tienen que producirse ya queremos que este traspaso no sea

útil que les sirva a jueces y juezas no nos olvidemos para tomar las mejores decisiones para lograr la reinserción y que les sirva a las personas penadas para preservar sus derechos y que se reintegren en la sociedad contra la que en algún momento

porque teníamos el trabajo adelantado y los deberes hechos porque desde el departamento de trabajo y justicia se habían venido contrastando modelos y porque dibujan ya la imprescindible colaboración que existe entre distintas áreas del gobierno

que es algo fundamental hoy y que va a seguir siendo esencial mañana

que ha atendido esta disposición al acuerdo y que ha incorporado una serie de propuestas que creemos que encajan

del modelo que mayoritariamente compartimos en esta cámara bien es cierto que ha habido una pequeña variación una pequeña

nos ha puesto en conocimiento desde la tribuna

pero en algunos casos creemos que nuestros grupos las han planteado mejor con mejor redacción o con mayor precisión y probablemente

pesaban una serie de cuestiones que no tenían que ver con lo que podemos hacer hoy o con lo que podremos hacer cuando asumamos las competencias en esta materia

en este debate así que esas propuestas de distracción en las que comentábamos cuestiones que no tienen que ver en realidad con el núcleo de la transferencia de la que hoy estamos hablando

rechazadas este pleno no está para atender las demandas de unos presos concretos de los presos de eta que por otra parte no están en cárceles vascas que es el ámbito de nuestra gestión y que en caso de estarlo porque así se decidiera por instituciones penitenciarias

un trato diferenciado del resto de la población reclusa así que las razones de rechazo a las propuestas de eh bildu las vamos a resumir en tres razones que en españa y en euskadi y en esto me voy a sumar a la portavoz del partido popular no hay presos políticos o de motivación política o similar

previa en ningún tipo de cuestión lo que hay y se lo han dejado muy claro lo hemos dicho también esta mañana pero se lo vamos a reiterar lo que hay son presos por delitos de terrorismo por matar por asesinar por extorsionar por secuestrar por eso están en la cárcel nos oponemos también a propuestas que dan por hecho que en las cárceles se tortura o se realizan prácticas degradantes

defendemos la dignidad la integridad de las personas presas y nos vamos a comprometer y nos comprometemos con esa tarea pero eso no pasa por asumir situaciones que si las hay

y no políticamente nos oponemos también a propuestas que pongan medio gramo de sospecha en los empleados públicos que desarrollan su actividad en los centros penitenciarios nos oponemos también a propuestas que establezcan categorías entre la población reclusa según su delito según el delito que hayan cometido

a propuestas que se refieran al modelo penal y no al penitenciario porque eso excede de nuestra competencia

en nuestras propias propuestas de resolución de estas le hablo ahora pero permítame este apunte

que de repente hacen ustedes señores de eh bildu no porque no nos alegre que por fin tengan un gesto de reconocimiento a la labor que realiza nuestra policía

sino porque lo que pretenden es deslizar aunque no lo digan así una suerte de contradicción entre funcionarios esos que

y los agentes de la policía autonómica y porque en resumen nosotros ya prevemos mecanismos de coordinación entre todos los departamentos concernidos del gobierno vasco incluido lógicamente el de seguridad y también con el resto de instituciones y con el tercer sector

las que hemos acordado con elkarrekin podemos y las que esperamos que también tengan el respaldo del resto de grupos de esta cámara empezamos

también en esta materia nunca sobra viendo además como hemos visto los vientos que soplan y las intervenciones desde esta tribuna por si a alguien no le ha quedado claro que esperamos que la transferencia se pueda materializar y que el próximo gobierno de españa mantenga su voluntad de llevarla a cabo y sabemos que esto será así si el gobierno es socialista

el basado en el consenso en la dignidad humana el orientada a la resocialización con plena garantía de todos los derechos que asisten a un preso y que no le hayan sido restringidos por sentencia

hay y es verdad una cuestión de forma en las propuestas que han presentado pero

formas y el fondo lo que tenemos es el consenso o compartimos ese fondo

hemos presentado con una forma correcta y que se basa en esto que yo le estoy diciendo ahora

de integración de políticas públicas todo eso también lo reclaman ustedes y que incorpore prácticas restaurativas y la perspectiva de género de forma transversal porque

determinados aspectos concretos de esas propuestas que ustedes nos hacen como pueden ser los módulos mixtos y nosotros apostamos igual por unas unidades de mujeres externas que se lo ha dicho además hoy también la consejera eso no debía ser una propuesta

no que queremos también apostar por un modelo que apueste por un cumplimiento de penas que contribuyan a mayor humanización

las propuestas que ha podido usted leer un modelo que garantice un acceso a los servicios de salud en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía nosotros hablamos del trato

que facilite el mejor tratamiento de las personas con enfermedades mentales y adicciones y aquí en el caso del compañero de elkarrekin podemos nosotros hemos llegado a transar una propuesta con ustedes que es la que hace referencia al punto treinta y ocho en la que hemos

de programas de tratamiento terapéutico psicológico y psiquiátrico específico en base a la experiencia ya acumulada de nuevos modelos terapéuticos para que se adecúen mejor a las personas drogodependientes y pacientes con problemas de salud mental grave con especial incidencia en aquellos presos que cumplen sus penas en régimen cerrado mejorando de este modo el acceso a las estructuras intermedias de rehabilitación en el ámbito de la salud mental

de contradictorio con nuestra propuesta en el punto cuarenta y tres en el que décimos es que también se impulsen el uso de las unidades psiquiátricas existentes

si eso nos posibilita un tratamiento fuera de la institución penitenciaria pero no creemos que sean excluyentes y por tanto tampoco comprendemos el por qué no

a ambas propuestas por parte de su grupo queremos que se potencie también

de ahí también el tercer sector nosotros lo que creemos imprescindible es que habrá servicios que se presten de forma directa como se están realizando en este momento también

es dotarles de los medios adecuados de la financiación adecuada para permitirles desarrollar en condiciones ese trabajo para la profesionalización la formación

ese desarrollo que del tercer sector con la prestación de servicios que también se realiza dentro de la gestión penitenciaria de forma directa por eso tampoco entendemos

no se quiere dar el apoyo también queremos lógicamente que este modelo potencie como el resto de grupos que han intervenido el cumplimiento de penas en régimen abierto

ese tránsito entre la prisión y la vida en comunidad y que garantice también la continuidad de los tratamientos que se han iniciado en ese proceso de resocialización y tratamiento que se realiza

condena y que se ofrezcan garantías suficientes al poder judicial para que puedan adoptar estas medidas alternativas al cumplimiento

cerrado y también es cierto queremos que se promueva su capacitación la adopción de hábitos laborales y la mejora de la empleabilidad que no sé si esto tiene que ver con lo que ha mencionado el señor uria con el tema de la cogestión cuando estuvimos en zaballa la cogestión nos la explicaron además con el tema de que

que los propios presos las propias personas que están en la cárcel colaboren en el mantenimiento de las instalaciones nos hablaron de jardinería nos hablaron

de la propia infraestructura no de forma obligada sino de forma voluntaria por la cual también recibían una retribución en este caso no tenía consideración de alta en seguridad social ni de contrato de trabajo para eso había que pasar a los módulos de

en el que también se elige por parte de la persona presa las horas que quiere trabajar porque

recogida de hábitos laborales que muchos de ellos no lo tienen por tanto no entiendo por qué contraponemos esa cogestión

en su propio proceso de reestructuración personal

no es incompatible son cosas complementarias y a diferentes niveles de actuación en ese sentido lo que creo

acuerdo si no nos distraemos con intereses oscuros ni con segundas intenciones si no hacemos trampa en este debate nosotros vamos agradecer desde luego la colaboración del partido nacionalista vasco el esfuerzo que se ha realizado también por parte de ellos de elkarrekin podemos

y también queremos agradecerle a eh bildu que nos haya dado la oportunidad de demostrar aquí

respecta que no hemos perdido ni medio minuto que hemos venido con los deberes hechos y con los papeles pasados a limpio por mucho

quienes hemos estado en la construcción de cada transferencia la gestión de cada competencia y la construcción de la euskadi que hoy conocemos

que tenemos claro también qué queremos con esta nueva competencia para qué la queremos y cómo la queremos así que vamos a dar por bueno desde luego este día en el que trasladamos a la sociedad

y esto en cualquier caso siempre tiene que ser o debe de ser una buena noticia de todas formas también comentarle una cosa señora goirizelaia que sería bueno que usted cuando

la consejera le ha dicho que tienen un informe que se ha realizado por un grupo de expertos y que en este momento está en el departamento en fase

no es que no lo tenga nada cerrado tal tiene un documento

y nos han troceado otro para presentarlo hoy en el pleno nada que cuestionar todo el mundo tiene su método de trabajo eskerrik asko castelo andrea eta amaitzeko

como ya ha adelantado la señora castelo los grupos parlamentarios nacionalistas vascos y socialistas vascos hemos presentado un total de cuarenta y cuatro propuestas de resolución en este pleno monográfico instado por eh bildu hemos transado dos con el grupo elkarrekin podemos y con eh bildu

alcanzado en esta materia porque la primera lo que hace es reclamar la necesidad y prioridad del cumplimiento de la transferencia

decíamos en la primera intervención esta mañana yo creo que es importante que nuevamente este parlamento se pronuncie y exija el cumplimiento de la ley exija el cumplimiento del estatuto

servicios penitenciarios señora llanos que abarcan a los establecimientos penitenciarios y de reinserción social no es que se renuncie a nada de lo que dice el estatuto y la segunda que también es importante porque se acuerda la necesidad de buscar un consenso

y el resto de sectores y reflexionar sobre el modelo que es lo que hoy hemos hecho aquí entendemos que es una tarea ardua compleja

decidiese cómo se va a gestionar el nuevo modelo penitenciario vasco

unas directrices de por dónde los grupos parlamentarios aquí representados queremos que ese modelo de gestión penitenciario propio se diferencia y básicamente era en la reinserción social frente a lo que estábamos comentando la sanción de la presión el castigo y la venganza estaba prevaleciendo sobre la reinserción social el resto de propuestas que hemos presentado bueno ha habido otras dos que hemos transado con elkarrekin podemos que luego mencionaré

hacía referencia a ello brevemente pues la perspectiva restaurativa de la justicia la mayor humanización

sociosanitaria y formativa reforzar los diferentes itinerarios

el principio importante el principio transversal de la perspectiva de género

analizando la totalidad de las infraestructuras carcelarias muchas de ellas de los año cincuenta y también bajo esa perspectiva de género

una actuación coordinada tanto a nivel interdepartamental del gobierno vasco como a nivel interinstitucional teniendo cabida también

y otras asociaciones sociales como sindicatos en materia de salud habíamos introducido ocho propuestas de resolución en las cuales creo que de lo que se trata es de potenciar y mejorar el servicio pionero

a nivel penitenciario ninguna otra comunidad autónoma del estado lo hace osakidetza consiguió en dos mil dieciséis ya integrar la sanidad penitenciaria con la sanidad comunitaria y en esa línea

terapéuticos son importantes y sí destacar que quizás debiera ser

reflexión o declaración por mi parte en este pleno pero la voy a adelantar que es la última la última propuesta de resolución

insta al gobierno vasco a que para la ejecución del modelo penitenciario así como para la elaboración de los planes y documentos que sirvan para adecuar y gestionar ese modelo penitenciario

por ser órgano competente para ello se tengan en cuenta todos los documentos elaborados con anterioridad las aportaciones de personas externas que han colaborado con el departamento de trabajo y justicia esta legislatura

respecto a las catorce propuestas de resolución planteadas por elkarrekin podemos hemos logrado una transacción en cuatro de ellas dos ya mencionadas que son los dos primeros puntos que consideramos de calado

nos ha sorprendido el posicionamiento abstencionista de elkarrekin podemos cuando entendíamos que había un acuerdo por el cual

propuestas de resolución y nosotros apoyábamos las suyas nosotros vamos a cumplir lo que habíamos acordado y vamos a apoyar las propuestas de resolución planteadas por elkarrekin podemos

de cara a la votación la treinta y seis a la que mencionaba es la treinta y cinco la cual

y lo que nosotros planteábamos es dotar de la financiación adecuada que creo que es una reivindicación

pero sí mejorar esa dotación la cuarenta y cuatro se refería a la cuarenta y cuatro que es la cuarenta y tres

referente a las unidades terapéuticas y aita menni no compartimos que no funcione aita menni de hecho nosotros lo que planteamos es estudiar la posibilidad de más plazas si es necesario

en cuanto a las nuevas formas de delito nosotros no hablábamos de narcotráfico únicamente nos referíamos a las nuevas formas de delito que el otro día la señora consejera nos explicó en la comparecencia los

por lo tanto cumpliremos lo acordado con podemos y votaremos a sus propuestas a favor

poco que decir estamos planteando y reflexionando cómo gestionar un modelo penitenciario propio vasco y eso vendrá cuando se cumpla la ley y se complete la transferencia y usted en el primer punto niega la mayor

dice que eso cuando se den las condiciones sociales oportunas que en este momento todavía

esto es una interpretación nacionalista del estatuto o es una interpretación nacionalista española del estatuto

el cumplimiento de la ley está sometido a la evaluación de los grupos político que estén en el gobierno nosotros tenemos claro que se trata de una ley orgánica del setenta y nueve

por tanto exigimos como hemos acordado el resto de grupos el cumplimiento

de manera prioritaria a la transferencia antes le mencionaba también en el pleno anterior no sé si

no sé si democrático que están evolucionando con esa moción que planteaban en el senado en la que proponían precisamente eso el incumplimiento de la ley el incumplimiento del estatuto pues van avanzando hacia lo que decíamos antes cuando se votó el estatuto en mil novecientos setenta y nueve que alianza popular

algunos se incorporaron en su partido y la unión nacional pues decía que

que eso está volviendo y que eso permite el que no se cumplan las leyes aprobadas y ratificadas en referéndum por la sociedad por otro lado

usted ha presentado creo que son veinte lo denomina propuestas de resolución pero

sino que simplemente son declaraciones podría servir para una declaración institucional pero no para un pleno monográfico con propuestas de resolución en las que se debe alguien en este caso el parlamento debe instar a alguien para que haga algo

afectada entonces ya sabemos ya

intuimos que a diferencia de lo que ha ocurrido con eh bildu en el caso del partido popular no es un error

hemos revisado las propuestas de resolución en el debate monográfico sobre fiscalidad y las propuestas de resolución

sobre la comunicación sobre la economía social y sus propuestas de resolución son

en este caso yo creo que intencionadamente no plantean propuestas porque no quieren de hecho niega la mayor y por tanto no hay intención política de

propio penitenciario propio en euskadi y finalmente respecto a las propuestas de eh bildu pues hemos transado dos como decía las dos primeras que creo que es importante alcanzado vamos a votar que sí a cinco de ellas a cinco de las propuestas y vamos a votar que no en principio al resto decía

yo creo que la mayor parte de esta sociedad y por lo tanto es evidente esa necesidad en segundo lugar decía que queda claro que todavía no tiene concretado el informe la señora consejera bueno

se hubiera dicho que lo ha hecho sin oír o sin escuchar a este parlamento yo creo que hay que dar

el procedimiento y los pasos que se están siguiendo hoy va a tener nuevas propuestas para incorporar

diseño de la elaboración del modelo de gestión y por lo tanto creo que vamos en la buena línea respecto a sus propuestas como decía usted decía que eran ciento quince esta mañana discutíamos o usted decía nosotros ciento quince ustedes solo cuarenta y cinco bueno pues como decíamos no se trataba de una cuestión de cantidad sino de calidad y también le decía la señora castelo que las propuestas de resolución tienen que tener sujeto verbo y predicado

es la forma y el fondo tan importante o más es la forma como el fondo y en el pleno del otro día también se lo decíamos a usted

haya que recordárselo es como si no identifica el órgano jurisdiccional al que pide la impartición de justicia presenta una demanda

quien lo haga decía que la mesa las ha admitida pues será por silencio negativo

pues hay que especificar entiendo yo quién es receptor de esas iniciativas

ochenta y dos es decir de las ciento quince entendemos que ochenta y dos no adoptan dicha forma sino

a tener en cuenta también pero que no reúnen esos requisitos que decíamos y ya le digo que algunas son aceptables en cuanto al fondo

y se tendrán en cuenta pero como le decía le voy a leer solo dos

la once por ejemplo la once interpreten todos ustedes si esto es una propuesta de resolución once el principio de territorialidad y localización se refiere a que las personas tienen que cumplir la presión cerca de su lugar de origen y du entorno familiar o social evitando el desarraigo pues bien como pronunciamiento

quién lo plantea a quién se lo plantea es una declaración de acuerdo

la dieciséis y solo voy a leer estas dos de las ochenta y dos que hay en este tenor literal

cada vez más fluida de la sociedad sus asociaciones y organismos populares e instituciones públicas con el preso

pero es esto una propuesta de resolución desde nuestro punto de vista no aquí no se está

lo insta ni a quién se insta ni quién es el receptor

de propuesta de resolución como ejemplos estos dos ejemplos no obstante como le decía en alguno de estos pronunciamientos sobre todo lo relativo

estamos de acuerdo con lo mencionado ya que la mayor parte de ellos por no decir todos

por otro lado muchas de las cuestiones que se plantean hacer ya se están haciendo y ello a pesar de no tener la transferencia en muchos casos vía convenio y sí es cierto que como todo

se está trabajando y para eso se demanda la transferencia plantean también en esas declarativas plantean la creación de estructuras organismos unidades como si no existieran

es analizar las que hay y ver si se pueden mejorar y optimizar lo planteado mucho de lo planteado

y las que existen pueden dar una respuesta satisfactoria si se tienen en cuenta esas necesidades reales de las personas afectadas

todo está por hacer pero esto como hemos demostrado esta mañana no es cierto tal y como hemos explicado no se parte de cero y la arquitectura básica de todo lo que hay que hacer cuando se reciba la transferencia está ya planificada el gobierno vasco ha adelantado ese trabajo una cosa que le comentaba antes y que se me ha olvidado esta mañana y se lo quiero

relativo a su insistencia en yo creo que en tres o cuatro de sus propuestas de resolución hacen referencia a ella al acercamiento

política penitenciaria que como hemos dicho es otra cosa distinta del modelo de gestión penitenciaria

sigue trabajando por el final de la excepcionalidad de la política penitenciaria

hitzeman y el plan de acercamiento de presos de eta a cárceles de euskadi entregado al gobierno español

se centran en el modelo de gestión de las infraestructuras penitenciarias y dentro de las cuestiones que dependen actualmente de las competencias

por eso les animamos a apoyar las cuarenta y cuatro propuestas de resolución que hemos planteado besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

sí muy breve señora presidenta hemos cumplido señor zorrilla no décimos no a ninguna propuesta ninguna nos hemos abstenido en algunas porque el grupo de trabajo que hemos hecho en elkarrekin podemos hemos invitado

de otras comisiones de empleo de derechos humanos de seguridad y hemos cotejado algunas cuestiones para no tener contradicciones es así de sencillo

es el apoyo al conjunto de propuestas de socialistas y del pnv agradezco a la señora llanos el esfuerzo de explicar sus propuestas y lo digo de verdad

asuntos formales y contradictorios que tiene

es interesantísimo que podremos llegar a algunos acuerdos en el futuro sobre todo en el marco de la transferencia y por último comentar que alexia castelo mi compañera pues que

no es cogestión lo que nos explicó el director de la cárcel de zaballa

en las labores de limpieza y en las labores de organización de la cocina y otras cosas no tiene nada que ver con procesos de toma de decisiones en los procedimientos de gestión de la cárcel

eso no es cogestión obviamente estamos totalmente de acuerdo con la idea de la participación y del voluntariado en el asunto pero bueno

señora presidenta yo lo que solicito si se puede y si no se puede quiero dejar constancia de esto es un receso para que el letrado que está o la letrada

lo son o no lo son y para que luego no haya ningún problema técnico jurídico de ninguna clase y no se utilicen argumentos extraños como silencio

entiendo que han sido admitidas y que se pueden proponer a debate exactamente igual si es posible solicito un informe y si no es posible

pues bueno pues quiero dejar constancia de que esta circunstancia es así

aiartza señora llanos no tenía ninguna duda de lo que iba a decir

porque efectivamente es verdad es decir nosotros queremos un sistema propio

cómo queremos que sea ese sistema propio que es diferente al suyo y por eso no va a votar nuestras propuestas nosotros tampoco las suyas

en relación con el partido socialista han hecho un trabajo por adelantado bueno

es un poco adelante sí pero un día nosotros les pasamos nuestro informe con anterioridad les pasamos todo les hemos pasado las propuestas bien sí un poco adelantado pero mire no entiendo lo que usted me dice yo me leo las propuestas

entender por qué no quiere usted votar la propuesta número dos

es que a mí me gustaría que se lean las cosas cuando hablamos de los empleados públicos propuestas dieciocho a veintisiete léaselas y verá que dice lo que dice que no estamos poniendo a nadie de nada estamos planteando medidas para que las cosas se hagan de otra manera y se hagan mejor y como nosotras sí tenemos coherencia y sí tenemos las cosas claras pues mire nosotras sí que vamos a votar que sí a las suyas porque le he dicho que coincidimos en el espíritu también se lo digo al señor zorrilla y que aunque no tienen la concreción y no plantean las cuestiones que nosotros planteamos pues nos parece

nuestras propuestas son más concretas las seguiremos trayendo las seguiremos proponiendo las pondremos encima de la mesa cada vez que podamos a través de proposiciones

pero aun así y todo vamos a votar que sí a esas propuestas hombre y hablaba a la mañana la señora llanos de propaganda electoral pues propaganda electoral

que nos ha dicho que esto irá mucho mejor si gana el psoe pero bueno

pues mire señora llanos yo si hago propaganda electoral llevo haciendo propaganda electoral desde el dos mil dieciséis desde que senté en la comisión y empezamos a hablar con la señora

en los mismos términos y planteándolo siempre igual porque sí que tengo una preocupación por esta cuestión porque mi trabajo se ha desarrollado en relación con esta cuestión

pusimos en marcha la comisión de derechos humanos y hemos trabajado siempre en relación con esto y me preocupan mucho la situación de los presos muchísimo porque muchos de ellos son mis clientes y están en unas situaciones muy preocupantes y por eso lo planteo y finalmente en relación con lo que nos dice

hombre margen del informe o el documento o no sé muy bien de la señora consejera

nos dijeron ustedes en la intervención de aquí creo que la señora castelo cuando se opuso a nuestra propuesta que estaban haciendo un informe

paciencia también pero creo que dos años es tiempo como para hacer un informe nosotros hemos hecho las comparecencias en un tiempo más o menos similar y todos hemos traído nuestras propuestas y todos hemos traído nuestros informes

sin gastar dinero o por lo menos tanto y haciendo las cosas como buenamente hemos podido tenemos un informe tenemos unas propuestas que hemos sometido a votación y que vamos a someter a votación y nos falta todavía saber

pues bueno tenemos mucha paciencia pero hombre lo que creemos es que esto si es urgente la transferencia es urgente saber cómo y de qué manera queremos hacerla y es urgente ese informe

gracias señora presidenta me quedo más tranquila también sabiendo que nuestras propuestas de resolución también han sido admitidas por silencio positivo en todo caso señor zorrilla porque el negativo suele ser para rechazar

de la reinserción y la rehabilitación que va a ser la finalidad qué es lo que está diciendo la finalidad fundamental qué es lo que está diciendo que no lo es en este momento y eso lo comparte el partido socialista que el sistema penitenciario español que como he dicho esta mañana ha sido ejercido por partido popular y por partido socialista según quién haya estado en el gobierno no tiene como finalidad la reinserción y la rehabilitación pero yo le voy a decir una cosa

pero también hay que tener en cuenta y se lo he dicho a propósito del debate de la prisión permanente revisable y que no vamos a

pero hay quien no quiere rehabilitarse quien no está rehabilitado quien no está resocializado y usted señor zorrilla qué propone que sin estar resocializado sin estar rehabilitado

para que vuelva a delinquir eso es lo que me está diciendo ese va a ser el sistema según usted de cumplimiento que no va a poder ser porque eso no va a depender de ustedes va a depender del juez de vigilancia penitenciaria que todavía

y ustedes hablaban del retroceso democrático y de nuestra capacidad gestionando comunidades autónomas o nuestra visión autonomista mire el partido popular gestiona más comunidades autónomas que ustedes

porque hay competencias que ustedes gestionan le tengo que recordar el informe pisa con educación

en problemas de otras comunidades autónomas

y han salido escaldados o le tengo que recordar la portada de un diario

que se le llama al señor lehendakari directamente mentiroso que mintió que mintió o sea que ya le digo una y de aquella manera y cuando se meten en otra salen

más que más autogobierno mejor autogobierno porque ustedes durante mucho tiempo la transferencia de prisiones le importó un comino un

y ahora no solamente esta todas las demás por qué las reclaman pues porque ustedes están en ese continuo mantra de ir contra el estado de victimismo

y de impedir la presencia se lo he dicho esta mañana del estado en euskadi van un paso más allá y ustedes hablan de retroceso democrático mire la moción que se aprobó en el senado no iba contra el estatuto en absoluto lo que iba era en contra de su interpretación del estatuto de su visión

pero ustedes aquí han votado en contra de la constitución en contra de la constitución quién tiene el retroceso democrático en esta cámara

esa bancada o esta porque de estos ya ni cuento claro y yo

la señora castelo ha dicho que si gana el partido socialista las cosas serían mejor para ustedes verdaderamente irán mejor irán mucho mejor

porque yo con qué me quedo de este pleno con quién va a pactar la transferencia de prisiones a euskadi el partido socialista

con el pnv que es su socio de gobierno

y con podemos esos son sus compañeros de viaje para pactar la transferencia de prisiones y el modelo penitenciario

los compañeros de viaje del partido socialista lógicamente qué van a hacer ustedes o qué ofrecen hacer

el gobierno pactar con los nacionalistas y con los independentistas y eso es con lo que yo me quedo y esto es su oferta electoral hoy usted también está en campaña y su oferta electoral es pactar

de prisiones el modelo penitenciario y lo que sea menester con los independentistas y con los nacionalistas ya les digo

cuando no hay más argumentos recurrimos al tema fácil mire míreselo quién se queda fuera quién es el único grupo que se queda fuera

que representamos al cien por ciento de la sociedad vasca quién se queda solo no quiera echarnos la culpa a nosotros de buscar el consenso el diálogo y la forma compartida de hacer las cosas háganselo mirar se están quedando solos

esto va con el cumplimiento de una ley

o decían hablamos del estatuto de autonomía y ahí se aclara perfectamente que esa competencia le corresponde

si hay un gobierno socialista tras las próximas elecciones generales la transferencia

del modelo para el cumplimiento de penas llegará al país vasco otra cosa será si hay otro resultado y usted sabe cómo yo

lo que puede pasar si hay otros porque tenemos la experiencia previa de acuerdo y no se asuste no se asuste

le hemos dicho que hay defectos de forma bajo nuestro punto de vista en sus propuestas y le ha puesto un ejemplo evidente el señor hombre si usted me viene aquí eso es lo del libro de santillana que me ha contado antes ustedes han cogido el libro de santillana y han dicho el principio territorial

pero eso es una propuesta de resolución o es el libro de santillana cogido a trozos

todas esas las hemos analizado bien es cierto que con el resultado de que apoyamos algunas otras no y algunas hemos transado

tenemos un baile de números de mucho cuidado hemos transado la dos entre tres grupos

en la tribuna y la verdad lo que vamos a hacer es votar que no

no vamos a hacer como ustedes cuando no les gusta una propuesta que se trae al parlamento que dicen en esta votación no voy en esta no lo hago

parlamento y vamos a votar no a estas propuestas que les hemos comentado vamos y además sin ningún tipo de complejo y con todos los argumentos y con todas la razones

y mire yo no sé si su propuesta estaba antes o no antes la mía el lunes la suya yo la recogí de la prensa el fin de semana maquetada preparada tipo

a lo que les interesaba era aquella presentación pública bien mona bien tal se han cuenta de que tenían que cambiar el formato para las propuestas de resolución les ha interesado bien poco

vamos está la propia corrección de las enmiendas por parte del grupo proponente que lo podrían haber hecho

porque ustedes no querían eso en cualquier caso yo voy a cerrar diciéndole que yo creo que usted dice que queremos saber cómo y para qué y creo que el cómo y el para qué lo compartimos en este parlamento y la verdad

hay que tener claro una cosa señora llanos cuando una persona que está en prisión sale y reincide es porque hemos fallado como sistema

tendremos que mejorar todos los mecanismos y tendremos que tener todos los instrumentos posibles para que esa reinserción se produzca y podamos por tanto mejorar la seguridad de las comunidad por tanto

hay acuerdo amplio con respecto a los principios los objetivos

compartimos que la transferencia tiene que llegar al país vasco y creemos también que sabemos para qué y que seremos eficientes en su gestión cuando esta llegue

elkarrekin podemos hombre para nosotros no es lo mismo estar de acuerdo que abstenerse y no es lo mismo apoyar

bastante importantes respecto a eh bildu

hemos dicho que para nosotros para nosotros tanto para el grupo nacionalista como el grupo socialista

bien claros de los ochenta y dos que recogen en los que

en muchas de ellas y no es como le decía a la señora castelo no es que no vayamos a votar

vamos a votar que no y creo que le hemos dicho que a pesar de que vamos a votar que no por el motivo de forma

pronunciamientos académicos que decíamos hay cosas que son aprovechables y aceptables y que instamos también al departamento a que las pueda tener en cuenta

de la dos y yo creo que aquí le ha fallado el subconsciente claro como juegan con dos documentos uno el documento para una audiencia y otro el documento que presentan aquí en la cámara la dos que decía usted la del movimiento contra la tortura prevención contra la tortura era

todos los grupos menos el partido popular o sea aclárese habla de margen de confianza y de paciencia bueno a nosotros nos va a hablar de paciencia y dice que van a votar a favor

sinceramente su voto positivo y tengo claro tenemos claro que si votan que sí si votan a favor es porque consideran que son buenas propuestas y así hemos trabajado y creemos también sinceramente que son buenas propuestas para marcar las líneas generales y las directrices de lo que tiene que ser el modelo de gestión penitenciario propio vasco respecto a la señora llanos estos han ido al revés

se han incorporado no voy a apoyar el estatuto ahora a defenderlo fervientemente

la prioridad de esta transferencia de competencias penitenciarias y ahora lo que propugnan es el incumplimiento de la ley

en criterios particulares o políticos particulares

lógicamente señora llanos lo que planteamos y creo que también en los objetivos estratégicos que decía la señora consejera coincidimos no es que todos los presos

lógicamente la prisión la prisión debe de ser decíamos antes

lógicamente si alguien ha hecho un hurto o un delito menor y por el motivo que sea tiene que ir a la cárcel lo que proponemos ese castigo se cumpla en una medida alternativa a la prisión que como se ha demostrado es más eficaz es más eficaz para el objetivo de la reinserción social claro si el objetivo como decíamos no es la reinserción social sino es el castigo y la venganza

tiene consistencia dice que les ha importado un comino esta transferencia bueno pues eso lo dice usted

pero nosotros y lo he dicho antes diario de sesiones de esta cámara

parlamento cortes generales puede repasar el diario de sesiones y ver cuál ha sido el posicionamiento del partido nacionalista vasco en esta materia siempre ha sido el mismo no ha cambiado

básicamente por dos cosas una porque están en la ley y porque han sido refrendadas por la sociedad vasca y otra porque nos corresponde legalmente por tanto entendemos que

se está yendo fuera de lo que es el marco democrático proponiendo el incumplimiento de una ley tan importante para euskadi como es el estatuto de autonomía